miembros del gobierno bueno hoy asistimos al debate del último presupuesto de esta legislatura

comenzó con acuerdos distintos con el

acuerdos tanto en el país vasco como en españa esos acuerdos dieron algunos frutos como fueron la estabilidad en los dos sitios el acuerdo del cupo que el tren de alta velocidad llegara al país vasco en el año dos mil veintitrés soterrado en vitoria y en bilbao la reforma del impuesto de sociedades

y se aprobaron varias leyes de este parlamento como la ley de puertos por ejemplo

desde que tenemos estatuto de autonomía se crecía más o menos sobre el tres por ciento y se creaba empleo

pero el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco decidieron cambiar de socios

y la excusa fue una sentencia por corrupción en un ayuntamiento de madrid por un tema de hacía quince años

que casualmente hace una semana conocemos una sentencia por corrupción en el país vasco que afecta a la diputación de álava y al gobierno vasco y yo no sé si la señora mendía está preparando una moción de censura

lo que procediera visto lo que se hizo en otros sitios

en este cambio de socios además de incorporar al partido socialista incorporaron a eh bildu y a podemos en madrid en álava en ayuntamientos de vitoria y esto dio lugar a lo siguiente por ejemplo que el tren de alta velocidad en el pacto que hizo el pnv con el presupuesto fallido del señor sánchez se le diera una patada para adelante de dos años

ahora ya no sabemos cuándo es esto debe ser parte de la agenda vasca del partido nacionalista vasco creo que era no al final la agenda vasca del partido nacionalista vasco no es el bienestar de los vascos

porque algo que era muy urgente y que tenía que venir en el veintitrés ya no sabemos cuándo viene

ni si será en el veinticinco que tampoco ni en el veintiséis ni en el veintisiete pero bueno estos son los efectos

el año pasado con los nuevos socios intentaron pactar con bildu los presupuestos

sí salió parte porque en la prórroga de los presupuestos que el señor consejero se negó a pactar con nosotros

subió la rgi que era la petición que planteaba bildu

aunque no dejó contentos a sus socios en otros sitios aunque sí también en esta cámara porque también hay que recordar

necesario del partido nacionalista vasco en el acuerdo de bases para cargarse el estatuto y la constitución acuerdo que sigue vigente

que nosotros sepamos y la excusa del gobierno vasco para no pactar con el partido popular esta vez han sido dos el partido popular plantea una reforma del irpf

según el señor azpiazu entre otros por cierto no nos ha preguntado en qué consistía nadie del pnv nos ha preguntado en qué consistía nadie nos ha preguntado cuál era nuestra propuesta porque es evidente que les importaba un comino

dos años atrás de la reforma del irpf ya no se iba a producir y ya no se va a producir salvo en aquellos casos puntuales que el señor

y también nos decían otra cosa muy curiosa y el señor consejero en la comisión

y la vulneración de los derechos de los prejubilados de la educación pública verdad de los profesores y profesoras son doscientos millónes eso quebraría las cuentas del gobierno vasco hombre

no eran doscientos millónes señor consejero pero visto que podemos ha pactado por doscientos millónes uno se extraña de que podemos renuncie a defender derechos sociales de los funcionarios pero más se extraña de que el gobierno vasco tenga capacidad

que cuando planteamos algo eso se cargaría el presupuesto no cumpliríamos con ningún criterio de europa

resulta que si se pacta con podemos sí se cumple no señor lehendakari doscientos millónes en un año oiga nosotros planteábamos en varios ejercicios

un raca raca de la oposición tanto de bildu como de podemos pero especialmente del señor martínez yo recuerdo al señor martínez durante dos años

que por qué pactaban con el partido más corrupto de europa oiga señor martínez y usted por qué pacta con el partido más corrupto de europa en madrid

aquí qué ha cambiado en sus criterios de actuación a lo mejor lo que ha cambiado

para que el que va a ser el vicepresidente del gobierno de españa

y todas sus enmiendas que yo le reconozco que hacen un esfuerzo un esfuerzo en fin

y esas cosas porque lo único que hacen es incrementar el gasto corriente del gobierno a las mujeres no va nada

más gasto corriente del gobierno hombre y del ecologismo ya hablaremos luego los presupuestos estos que son los más ecologistas y los que más van a combatir el cambio

el pacto los pactos de estos últimos años el gobierno vasco la verdad es que desde el minuto uno se planteó que le daba igual pactar con cualquier grupo

es lo mismo pactar con el partido popular que con bildu o podemos que más o menos

pues un tanto curiosa curiosa por no decir preocupante por qué porque nos está llevando a un modelo en el que los tres principales problemas que según el señor lehendakari teníamos al inicio de la legislatura existen pero agravados el de la natalidad

de este gobierno es clamoroso en estos cuatro años si lo miramos por resultados cero o menos

nota más abajo del cero hemos crecido hemos apostado nosotros somos el único grupo que hemos hecho propuestas oiga les hemos dicho oigan pongan la universal tampoco cuesta mucho

qué modelo de sociedad pretende el partido nacionalista vasco le voy a decir en qué consiste el modelo al que estamos yendo mire hay unos que trabajan pagan impuestos baten el récord de recaudación pagando impuestos cotizan y hay otros que no hacen eso

se está creando un sistema que a la gente que no cotiza

pero tiene derecho a subvenciones lo cual está muy bien pero resulta que el que entra en el derecho de subvenciones no puede salir porque no se le deja salir señor lehendakari si usted cobra una rgi de setecientos euros y le ofrecen un trabajo de novecientos o mil

tiene que trabajar siete días a la semana

yo se lo pregunto porque el modelo de sociedad que además hay fraude pero el modelo social al que se está yendo es este y

esos que pagan impuestos que teóricamente tienen derecho por ejemplo a elegir la educación de sus hijos en la concertada a la que ustedes

eso sí de acuerdo con el modelo social de estos señores que consiste en cargarse a la concertada

con este modelo de sociedad que no es el nuestro para nada pero para nada no es lo mismo pactar con unos o con otros aunque al señor lehendakari le dé absolutamente igual a lo mejor no tiene ningún modelo de sociedad

hablando de humanismo cristiano pues que baje dios y lo vea a ver por dónde anda ese humanismo y el cristiano

el que entra en una vivienda protegida no puede salir no puede salir del sistema que se está creando de viviendas protegidas

no puede y qué puestos de trabajo se están creando en estos dos últimos años

porque dije que el cincuenta por ciento de los puestos de trabajo que se han creado han sido para extranjeros a mí me parece muy bien

ni mejor remunerados porque yo no sé si soy un extraterrestre señor lehendakari pero yo a los extranjeros que veo que vienen a trabajar aquí no veo que vayan de directores en las grandes empresas de este país

y básicamente en el sector doméstico que es donde por cierto se ha creado mucho desempleo que luego por cierto

se le llena la boca hablando del fraude fiscal lo cuantifican ustedes sabrán porqué y en cuánto y está muy bien combatir el fraude fiscal y el resto el resto no con el resto se puede convivir

es evidente que no es el nuestro este presupuesto que se va a aprobar hoy y el señor azpiazu lo sabe y por eso lo ha pactado como lo ha pactado

durante muchos años porque solo consolida el gasto corriente del gobierno vasco lo incrementa y el pacto con podemos lo ha empeorado sustancialmente si prácticamente lo que hace de todas sus enmiendas

que por cierto ya veremos en qué se lo gasta pero evidentemente se lo va a gastar en gasto corriente del propio gobierno vasco eso sí

por la igualdad o para el cambio climático cambio climático por cierto

señores consejeros del ramo señor la directiva del agua

si usted cobra en la toma de origen cómo lo reparte

que esto atenta contra esa directiva del agua que esto no es una tasa ecológica o similar

simplemente efecto recaudativo y cuanta más agua se desperdicie

y encima no depende de los ciudadanos depende de que los consorcios

hagan las cosas bien o hagan las cosas mal señor martínez este presupuesto es más ecologista que los anteriores

por no hablar de la sociedad de hidrocarburos que el otro día se habló aquí bastante

que incrementa la cuantía con la que partía esa sociedad luego dentro de la sociedad ustedes sabrán qué han enmendado pero del gobierno a la sociedad incremento de la partida no nos parece que sea el mejor

para combatir el cambio climático de una sociedad que no aporta nada salvo que nos cuesta mucho dinero desde hace muchos años y es de lo que se podría denominar

el presupuesto era malo lo dijimos en nuestra enmienda a la totalidad y ahora ha empeorado sustancialmente

crea unas bases que van a ser muy difíciles y muy complicadas de modificar yo no le veo a ningún gobierno en este año la rgi va a subir más del siete coma cinco por ciento de marzo a diciembre

el gasto corriente que ustedes se están consolidando yo no le veo a ningún gobierno rebajándolo

manteniendo los recortes que en su día se hizo a determinados colectivos de funcionarios pero luego

en fin no hay ningún problema en a otros que están ahora incrementarles los sueldos incrementarles las aportaciones a los fondos de pensiones y todo eso consolida mucho gasto verdad señor consejero claro de cada cien millónes cincuenta

cosa que en la calle esos que pagan los impuestos los que cotizan nadie se le ha subido el sueldo como este gobierno lleva haciendo en estos dos últimos años ni al personal que trabaja para el gobierno ni a los que reciben subvenciones del gobierno

conocen ustedes a alguien que le hayan subido el siete por ciento o más del siete coma cinco por ciento

por ciento como los funcionarios en alguna empresa de estas

sus impuestos yo no conozco yo no conozco porque alguno podría pensar que este es un gobierno de funcionarios y para funcionarios pero no todos son funcionarios porque si una de las novedades de este presupuesto porque los funcionarios del gobierno ya cobran trienios

altos cargos o miembros del gobierno que no son funcionarios y esos

señor consejero cuál es el concepto cuál es el concepto alguien puede estar en el gobierno vasco ah bueno si es del pnv igual sí

viceconsejeros altos cargos personal de confianza pero solo el planteamiento de que un cargo político pueda cobrar trienios es paradójico

me parece más paradójico ustedes venían aquí a salvarnos a todos de la corrupción de las élites eran ustedes los que iban a limpiar

el presupuesto el presupuesto más chungo hablando

y se lo va a comer con los partidos más corruptos de europa de españa y de euskal herria

es lo que toca es lo que toca porque claro cuando el pacto viene de madrid pues viene de madrid

me hace gracia es que intenten vendernos que es un pacto que va a mejorar mucho la calidad de vida de los ciudadanos yo le aseguro

los ciudadanos vascos con este pacto que ustedes han hecho las mujeres con este pacto que ustedes han hecho van a estar peor que hoy van a tener menos trabajo

y van a tener peores trabajos que los que tienen hoy porque no hay ni una sola medida real que fomente eso que le estoy diciendo o que fomente el combatir la brecha salarial la brecha salarial no se combate

todos cobrar lo mismo la brecha salarial está en la calle

cuánto dinero va a ir a la calle a los ciudadanos para combatir no no no digo a los ayuntamientos

para combatir eso a ayudas a la conciliación de verdad de las mujeres que trabajan y cotizan de verdad para que no tengan esa diferencia de salario y puedan trabajar las mismas horas

a eso cero nosotros

nosotros apostamos por un modelo de sociedad de ciudadanos libres un ciudadano libre significa que elige

y tiene derecho a elegir la educación por cierto que está en la carta de derechos humanos está en la constitución española está en el pacto del pnv con podemos pero qué aportan cero euros tiene congelado el módulo

once años congelado y el módulo para pagar a los profesores la subida es del cero coma ocho por ciento señor consejero lo he revisado tres veces porque usted me dijo no no es así pues oiga y lo he dado a otros para ver a ver qué porcentaje sube oiga el cero coma ocho por ciento

luego en la prórroga lo subió como los funcionarios pero en el presupuesto trajo el cero y ahora ha traído el cero coma ocho cero coma ocho sí sí señor consejero sí

accede a puestos de trabajo bien remunerados

y que pueda optar a tener una vivienda pero una vivienda

que entra en esa rueda y luego no puede salir porque yo no sé si ustedes saben

cambian bastante las nuevas generaciones

muchas veces porque les apetece pero otras por necesidad alguien que entra en el sistema de la vivienda protegida está fundido

y en el otro sitio no accede a ninguna por qué porque están creando ustedes un sistema de ciudadanos atrapados

a mí me parece que el mejor sistema de protección social es aquel en el que la gente no necesita tener protección social porque trabaja y vive de su trabajo

cuando nosotros decíamos que el mejor sistema de protección social es el empleo el empleo evidentemente de calidad

para fomentar el empleo de calidad las inversiones del gobierno vasco por ejemplo que es el presupuesto menos inversor de toda la legislatura el menos inversor entre otras cosas porque la inversión de madrid se ha caído

bueno lo de lo de los trenes de la margen izquierda y todo eso esto es una broma es una broma supongo que seguiremos

y poco más porque de hecho no se está haciendo nada más y hoy me ha dicho la gente que sea breve voy a ser más breve y voy a ir acabando es evidente señor lehendakari que la deriva

en la que están ustedes es una deriva que sí afecta a los ciudadanos sí afecta a la calidad de vida de los ciudadanos sí afecta al modelo de sociedad por lo menos a que nosotros aspiramos y que nosotros queremos defender

con sueldos dignos con libertades reales con libertades reales oiga ustedes se imaginan osakidetza

este gobierno se lo ha planteado alguna vez últimamente el imq sale mucho en los

no paga de más de lo que ya tenía que tener gratis total porque paga sus impuestos

porque aquí hay ciudadanos que pagan impuestos teóricamente tienen sanidad gratis

teóricamente tienen educación gratis para sus hijos y poder elegir el modelo

y hay otros como le he dicho señor lehendakari que no pagan pero tienen derecho a todo y hay otros que pagan y tienen que seguir pagando en lo privado para tener esos derechos

no va por el buen camino señor lehendakari y cómo no va por el buen camino pues qué quiere que le diga

sustancialmente empeorado con las enmiendas de podemos es que creo que no hay ninguna ninguna que vaya

a fomentar la creación de empleo la libertad de la gente no

todas son lo contrario yo entiendo que quieran ustedes una sociedad domesticada con ciudadanos domesticados pero como ese no es nuestro modelo de sociedad nosotros aspiramos a otro modelo de sociedad que básicamente es el que hemos tenido los vascos durante bastante tiempo

llegamos hoy al último trámite para la aprobación de los presupuestos del gobierno vasco para el dos mil veinte

el grupo socialista tal y como dijimos en el debate de enmiendas a la totalidad venimos

de dar nuestro apoyo a un proyecto presupuestario que lejos de todo el argumentado por la oposición hoy una parte que ya hemos escuchado que es lo que representa el partido popular y que después escucharemos por eh bildu va a consolidar el marco de estabilidad y de progreso

de nuestro partido para que desde la acción de gobierno se atiendan las urgencias inmediatas de euskadi y que se pongan los pilares para afrontar los retos de futuro esto es lo que significa este presupuesto un presupuesto que le pese a quien le pese

que muestra el compromiso y la responsabilidad de este gobierno bipartito con la sociedad y con las prioridades de esta sociedad un presupuesto que recoge partidas económicas que harán posible la consolidación del programa de gobierno que acordaron al inicio de la legislatura el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco

para la recuperación económica la creación de empleo y el mantenimiento de los servicios públicos la sanidad la educación y la protección social un presupuesto que consolida derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanos vascos porque consolidando derechos

los socialistas llegamos de nuevo a este debate final de presupuestos con la misma sensación con la que hemos llegado las dos anteriores ocasiones durante esta legislatura

y que hay mucho pero mucho mucho de despechos partidistas de quienes sostienen hoy aquí sus enmiendas parciales por un lado nos encontramos con el partido popular

y hoy aquí ha dado su versión como digo yo de argumentario propio interno

ni comprometerse con los problemas de la ciudadanía vasca tal es el despecho que ustedes sienten que llevan meses instalados en la máxima de que al gobierno ni agua aunque para ello tengan que hacer como hoy auténticas biribilketas verbales

sus negativas sus no por el no hoy ha estado usted aquí argumentando por un lado

provoca una sociedad de subsidiados pero por otro lado tenemos datos que demuestran que hay menos demandantes

eso es porque hay mayores oportunidades de empleo pero luego usted nos dice que no creamos empleo y que lo que se crea no es de calidad bueno usted sabrá cómo mantiene sus argumentos para mí su consigna es la consigna de los despechados la única bajo la cual le puedo entender

a pactar las cuentas y las políticas sectoriales con todos los grupos parlamentarios de esta cámara sin vetos ni exclusiones una máxima que como grupo

en todas y en cada una de las negociaciones parlamentarias que venimos desarrollando en esta cámara

porque los socialistas hemos tenido y tenemos claro que lo prioritario es la negociación sobre todo en la negociación presupuestaria

no tenemos vetos nos hemos abierto desde el inicio de la legislatura a pactar con quien quiera compartir y aportar respuestas a las necesidades de los y las ciudadanas

una estrategia y una actitud en la que no está ni se le espera al grupo popular ustedes sabrán a no mucho tardar deberán dar cuentas a la ciudadanía y ya veremos cómo valoran los ciudadanos este largo despecho que ustedes mantienen

y del acuerdo y que se ha de ser consciente que cuando un actor se retira de la escena

deja el camino expedito para que otros actores entren en escena y decidan participar y llegar a acuerdos y marcar sus prioridades una oportunidad que este año por fin ha decidido aprovechar una parte de la coalición de elkarrekin podemos sus enmiendas las del grupo popular destilan

en el debate de totalidad que sustanciamos el pasado día dieciséis una clara aversión a lo público

a la protección de quien más lo necesita les sobran trabajadores públicos y así presentan enmiendas para reducir las partidas para la contratación de profesores y maestras eso sí profesores y maestras de la escuela pública

en sus enmiendas no hay que cubrir las bajas que se produzcan acaso pretenden que el gobierno por el artículo treinta y tres establezca que ninguna profesora se puede poner enferma o es que acaso ningún profesor puede pedir excedencia para conciliar esa vida familiar

algunas de las enmiendas que ustedes han presentado no a los sueldos de los sustitutos no a sus cotizaciones sociales y no es la única partida que afecta en la materia de educación

les sobran a ustedes las campañas de becas lo mismo que les sobran las indemnizaciones de los miembros de los tribunales eso a pesar de que sean derechos reconocidos al partido popular no le interesan esos derechos reconocidos ahora eso sí

los que no están en activo porque los que están en activo pues no son necesarios

a dónde los lleva pues a la obsesión que ustedes mantienen a la financiación de la concertada

y que estemos muchísimo más convencidos de compartir la parte que elkarrekin podemos pide de refuerzo de

basan sus enmiendas como siempre en el recorte e incluso en la supresión de lo que ustedes llaman

que consideran siempre excesivo e innecesario así que proponen en sus enmiendas pues que dejemos a la mínima expresión por ejemplo otra de sus obsesiones que es la partida de gasto informático da igual el departamento

uno de los departamentos del gobierno da igual que detrás de estas partidas se encuentre la receta electrónica la interoperabilidad de sistemas sanitarios el expediente electrónico la renovación de equipos o incluso los tóneres de las impresoras para ustedes todo es superfluo ahora sí

pidiendo la administración sin papel el expediente judicial electrónico la tramitación telemática de los atestados de la policía

la verdad toda una coherencia la que están demostrando últimamente la misma coherencia que demuestran cuando ustedes se suman a todas las proposiciones no de ley

pero sus enmiendas se dedican a reducir las partidas de emakunde para la asistencia a la comisión institucional

o la coordinación la asistencia a la coordinación de protocolos de atención a estas personas todo esto señores del partido popular es entre otras muchas cosas lo que se esconde entre sus enmiendas una coherencia señor damborenea que les ha llevado incluso a votar no en comisión

que todas las enmiendas de elkarrekin podemos empeoraban el presupuesto pues hágaselo mirar porque compartían ustedes algunas yo le voy a mencionar solamente dos

tenía que ver con el incremento de las partidas que se destinaban a la asistencia jurídica gratuita en coincidencia con elkarrekin podemos

no otras coincidían en los programas de empleo pretendían el refuerzo de algunos programas de empleo para colectivos vulnerables elkarrekin podemos presentaba las mismas enmiendas su voto en comisión no

no no y no están enfadados y como dice mi sobrina han decidido no respirar pues ustedes sabrán y en el otro extremo

pues nos encontramos con los de siempre con eh bildu

que ha decidido que prefiere mantenerse en la zona de confort de sus escaños pues para no mojarse ni con nada ni con nadie

aquella de la que se retiraron en el último suspiro entre sudores y escalofríos que sentían de pensar en saltar al ruedo y dejar el refugio de los escaños de esa oposición dura y pura que vienen ejerciendo décadas y décadas este año eh bildu no se lo tuvo ni que pensar que en la cueva ustedes están mucho más calentitos

fue clara desde el principio nos vamos a máximas criticamos a quién se moje sin que se nos note mucho el despecho aunque yo creo que sinceramente esto no lo han logrado porque se les nota y se les nota muy dolidos y como mi compañera susana ya les explicó en el debate de totalidad

señores de eh bildu los partidos nos esforzamos

y es la ciudadanía la que concede o no concede mayorías absolutas

lo que nos están exigiendo o cumpliendo esa que pactemos a que lleguemos a acuerdos entre diferentes y para eso para llegar a acuerdos entre diferentes hay que ser capaz

los socialistas asumimos cuando pactamos que no podemos llevar adelante todo nuestro programa y que nuestro esfuerzo se debe de centrar en orientar las políticas públicas

a nuestras propuestas aunque ello suponga avanzar de una forma más lenta y así es como se consigue conducir la acción de un gobierno

en cohesión social este principio básico es muy sencillo y se llama principio de realidad ese principio que ustedes solo practican

y no hace falta que les recuerde cuáles son las políticas que ustedes aplican o cuáles son las máximas que ustedes utilizan en aquellos sitios en los que alguna vez han gobernado verdad

o en navarra porque yo me he cansado de buscar y no los encuentro pero como les decía el principio de realidad para ustedes no tocaba ni otros años ni por supuesto toca este lo que les toca hoy y lo veremos cuando

es exhibir sus esencias airear sus máximas y reivindicar la patria por encima de las personas si total no hay intención de negociar

que lo que se busca no es influir sino que lo que buscamos chicos es otra cosa los ansiados titulares de prensa

el complemento de pensiones la indexación de la renta de garantía de ingresos al salario mínimo interprofesional

propuestas que hay que recordarles que ni se asomaron la patita el año pasado cuando ustedes se arremangaron un poquito las perneras del pantano e hicieron un simulacro de negociación

que lo que ustedes plantearon y lo saben perfectamente fue un porcentaje sobre lo existente lo mismo que este año ha logrado otro grupo

lo que hacía su propuesta era pasar por la mejora de programas

jóvenes programas locales de empleo y colectivos vulnerables precisamente y casualmente mejoras que se han introducido en este presupuesto por otros grupos y así es que es la política el hueco que dejan unos pues lo aprovechan otros

con muchísima más efectividad de cara a los vascos y las vascas que estos guardadores de las esencias que tenemos en este parlamento en lo concreto de sus enmiendas las de reducción pues las han presentado de forma genérica algunos departamentos son casi un clásico de ustedes o sea yo el día que revise el presupuesto del gobierno vasco y no me encuentre una enmienda de reducción en la ertzaintza me sorprenderé me sorprenderé sesenta y tres millónes de euros menos esa ertzaintza a la que luego le piden eso sí

la quieren recortar sus recursos o en la administración de justicia un servicio para el que no se cansan en pactar en este parlamento la mejora de su atención por ejemplo para las víctimas de violencia machista pero a la que ustedes destinarían muchísimos menos

enmendar alejados del principio de realidad y pensando en otras cosas en las enmiendas del incremento del gasto pues como les decía las enmiendas de titular

complemento de pensiones establecimiento de un salario mínimo con boina sus enmiendas verdes las enmiendas moradas en fin todas estas lo de menos de sus enmiendas

competencial o no no les interesa o en el instrumento presupuestario que utilizan o no tampoco les interesa eso para ustedes hoy no tiene importancia

y luego veremos cómo utilizar su turno saben ustedes que todas ellas

una y otra vez con las iniciativas que han traído a esta cámara y en todas y cada una

los socialistas les hemos dado nuestros argumentos y no nos hemos cansado de repetirle una y otra vez cuál es nuestra posición sobre el sistema público de pensiones

entre vascos gallegos asturianos o catalanes ni tampoco nos cansaremos de repetir a quién le corresponde la negociación colectiva y que tenemos que respetar y a quién le corresponde establecer los salarios de convenio una y otra vez nos han escuchado pero ustedes es igual

que lo importante son las esencias y no las influencias

por tanto yo sí que voy a ser breve y voy a ir terminando

ustedes no lo quieren practicar finalizo como finalizó mi compañera en el pleno de enmiendas a la totalidad teniendo claro muy claro

como eh bildu podremos decir alto y claro a la ciudadanía

van a contar con unos presupuestos que sostienen nuestros servicios públicos y nuestro modelo de protección que sostienen los planes de empleo que atienden los retos climáticos y que tienen presente la igualdad como un eje transversal de todas las políticas que despliega el gobierno vasco

que ha merecido la pena implicarse sin complejos con convicción

para que se nos pueda decir que tenemos esa fe inquebrantable y esa fortaleza de los guerreros templarios en el compromiso con los ciudadanos y las ciudadanas

que queremos ofrecer estabilidad la estabilidad que necesitan porque a pesar de todos los malos augurios que desde aquí lanza el señor damborenea o de todos aquellos augurios que se anunciaron hace tres años la realidad ese principio de realidad

estamos mucho mejor pertrechados y preparados para afrontar cualquier incertidumbre futura por tanto hoy cuando acabemos

los titulares de prensa que algunos vienen buscando podremos decir que tenemos un instrumento para consolidar las políticas públicas para consolidar los servicios públicos
y para afrontar mejor los retos de futuro eskerrik asko

en el año dos mil dieciséis tras aquella crisis económica que tantos derechos se llevó por delante y adquirimos

el primero era batallar para revertir las políticas de recortes ejecutadas con la excusa de la crisis y el segundo plantear un modelo alternativo desde la izquierda a la lógica

que fueron ideadas y puestas en marcha con la argumentación de la necesidad en tiempos de crisis por lo tanto faltaríamos a nuestro compromiso si no los rechazásemos son medidas que llevamos años criticando como saben ustedes perfectamente y que no deberían mantenerse si de verdad fueron creadas como excepcionalidad en tiempos de crisis faltaríamos también a nuestro segundo compromiso si respaldásemos unos presupuestos que no han visto modificada su lógica respecto a los años

hace un año decíamos en este mismo parlamento plantear una alternativa desde la izquierda al modelo político y económico de este gobierno no es pedirle equis millónes plantear una alternativa desde la izquierda al gobierno no pasa por aceptar los presupuestos a cambio de unos millónes

que no se va a dar con los presupuestos esto que decíamos hace un año vale para estos presupuestos de dos mil veinte en opinión de ezker anitza izquierda unida y por lo tanto esta sigue siendo nuestra opinión y nuestra posición

las desigualdades sociales son cada vez mayores en euskadi tal y como constata la encuesta de pobreza y desigualdades sociales por lo tanto nosotros no compartimos el modelo no es nuestro modelo es un modelo presupuestario que potencia el desarrollo injusto

un modelo basado en el trasvase de recursos públicos a lo privado a través de conciertos y contratas que luego facilitan la generación de clientelismo e incluso

hablar de esta cuestión se renuncia a crear empleo de calidad limitándose a fomentar empleos temporales vía subvenciones y sobre todo en euskadi las rentas de los propietarios capitalistas y los beneficios de las grandes empresas

de la clase trabajadora cada vez tienen menos peso este es un dato objetivo

como el consejo de relaciones laborales en euskadi los capitalistas cada vez ganan más mientras las y los trabajadores cada vez ganan menos o cada vez pierden más ante esto el gobierno concedió al partido popular una rebaja del impuesto de sociedades

unos presupuestos mientras a la izquierda nos sigue diciendo que cuando hablemos de presupuestos no se va a negociar la fiscalidad así que a riesgo de ser nosotros volvemos a denunciar la hipocresía de este planteamiento dígase claramente no quieren reformas fiscales que le metan malo al capital y alivien a la clase trabajadora el modelo rementeria con este planteamiento en nuestra opinión se renuncia a utilizar las políticas públicas como verdadera herramienta de distribución de la riqueza relegándolas a cubrir las necesidades básicas de la población a través de unos servicios públicos donde lo privado cada vez más presencia seguimos por lo tanto diciendo lo mismo que otros años estos no son nuestros presupuestos estos no son

nosotros es evidente no compartimos los presupuestos ni compartimos el acuerdo al que han llegado nuestros compañeros de grupo parlamentario tampoco necesitamos ni vamos a sobreactuar creemos que con el mantenimiento de nuestra posición con nuestro discurso y con nuestro sentido de voto somos coherentes y vamos a seguir trabajando

indispensable para cambiar esas lógicas que décimos que queremos cambiar y que dijimos que queríamos cambiar cuando llegamos a este parlamento eskerrik asko eskerrik asko

itxaropen falta no hay duda que es un momento en el que la manera de que afrontemos los retos globales y los retos propios

por lo tanto la política vasca se enfrenta al mismo dilema que la política global

o avanzar inmovilismo o impulso y las fuerzas políticas deben decidir qué postura deben de tomar en la construcción del futuro

o bien ser parte activa desarrollando propuestas para modelar el futuro

creo sinceramente que la responsabilidad de las fuerzas políticas vascas

es la de ser capaces de desarrollar las mejores soluciones a situaciones

y yo creo que esta es la clave acordar para avanzar entendemos que el momento político y social tanto vasco como estatal como internacional exige a los partidos altura de miras para construir conjuntamente crece la desafección el hartazgo y la percepción ciudadana de que los partidos políticos son parte de un problema y no de la solución y en elkarrekin podemos queremos hacer política que debate

por nuestros principios de transformación durante estos tres últimos años hemos dejado claras cuáles eran nuestras prioridades como oposición y cuáles eran los retos de euskadi

no le va a quedar ninguna duda de que los doscientos como uno coma cinco millónes de euros del acuerdo

protección social servicios públicos políticas feministas lucha contra la precariedad

de nuestro modelo productivo ni nos conformamos ni perdemos de vista la euskadi que queremos construir

influimos directamente en las líneas políticas mediante una oposición constructiva

y estamos decididas a trabajar en medidas solventes para que esta vez la recesión económica

por el camino hemos logrado que se incluyan medidas como la subida de la rgi en un cuatro por ciento el doble de lo planteado inicialmente y que nos permite ser facilitadores de una subida total de un siete coma cinco por ciento interanual en dos mil veinte un ocho coma cinco por ciento para pensionistas

reduciendo las tarifas de las haurreskolak un diez por ciento en dos mil veinte y otro diez por ciento adicional en dos mil veintiuno

y abriendo nuevas aulas en los próximas meses en los lugares donde existe necesidad y preocupados por el posible deterioro de la calidad de la atención primaria en osakidetza hemos conseguido que se abran noventa y dos plazas de

para mejorar la atención en los centros de salud con más necesidades

de salud mental para niños niñas y adolescentes para proteger a las pymes y empresas vascas hemos conseguido que se cree un fondo de diez millónes de euros para la estabilización de empresas y pymes viables

debido a la inestabilidad económica medidas de reactivación y digitalización para el pequeño comercio local y varias partidas destinadas a apoyar a las personas autónomas para facilitar que nuestra juventud tenga la posibilidad de construir un proyecto de vida se incluyen medidas orientadas

a combatir la precariedad laboral en sectores uberizados a facilitar la empleabilidad de las personas jóvenes

como consecuencia del negocio de las apuestas y los juegos de azar eta krisia bistatik galdu gabe gauza izan gara aurrekontu hauen norabidean eragiteko

bi abiadurako euskadi honetan tal y como apuntaba recientemente

la desigualdad social crece en euskadi que ya es una de las comunidades autónomas más desiguales

se encuentra en riesgo de exclusión social y cada vez hay

de percibir un salario los empleos

como en nuevos sectores estratégicos como la digitalización o la sostenibilidad

como las zonas rurales y los municipios vascos más pequeños que sufren especialmente esta situación al contar con menos infraestructuras menos inversiones y peores servicios

la indiferencia que pueden ejercer algunas instituciones ante esta situación supone un lastre para euskadi que no nos permite avanzar como país eta ziur gaude gure akordioak

el siglo veintiuno avanza la igualdad efectiva de las mujeres en nuestra sociedad es un reto que no puede esperar más

ha tomado un impulso sin precedentes consiguiendo poner la vida en el centro de las prioridades políticas y demostrando que euskadi aspira a ser

y desde elkarrekin podemos llevamos cuatro años trabajando con esa misma determinación para poner también a las instituciones vascas a la altura de los tiempos pero todavía queda mucho trabajo por hacer

hoy en euskadi siguen produciéndose quince agresiones machistas al día

al tiempo que casi la mitad de las agresiones en el hogar siguen sin denunciarse las instituciones deben dar un trato digno a las víctimas de violencias machistas desde el momento en el que las padecen y volcarse en la prevención para evitar

se repitan otros treinta asesinatos como los cometidos en la última con este acuerdo hemos conseguido un paquete de quince medidas con las que el gobierno vasco se compromete a mejorar los sistemas y protocolos de atención a víctimas de violencia machista con una mayor inversión presupuestaria y a destinar recursos para la prevención de dichas violencias por otra parte no podemos negar que las violencias machistas tienen su origen en la desigualdad económica y social y por eso hemos considerado prioritario incluir medidas que servirán para impulsar

promover su contratación en sectores altamente masculinizados mejorar la empleabilidad de las mujeres profesionales e iniciar el reparto social de los cuidados para que podamos impulsar otra forma de organizar socialmente el trabajo de los cuidados que a día de hoy recae de forma mayoritaria y a menudo invisible sobre las mujeres por ejemplo con el plan elkarrekin zaintzen

de las haurreskolas de cero a tres años alabaina berritasuna ez dago bakarrik

y el consenso de la sociedad vasca para afrontarlo de forma urgente y ambicioso es por lo tanto el momento de pasar de las palabras a los hechos es el momento

nuestras cotas de bienestar construyendo un país tan sostenible como socialmente justo cuanto antes lo hagamos

y aprovechar como país las oportunidades de liderar sectores sostenibles e innovadores pero para ello

para poder avanzar puesto que este reto no puede esperar más desde elkarrekin podemos nos hemos sentado a trabajar sobre esa base y hemos logrado mejorar

en la base para una transformación ecológica de la economía vasca que no deja a nadie atrás en primer lugar hemos conseguido que los presupuestos vascos dejen de remar en la dirección contraria

explorando nuevos yacimientos de energías fósiles contaminantes queremos que este dinero pueda invertirse en desarrollar energías renovables y que el gobierno vasco ejerza su responsabilidad de liderar la transformación

destinadas a preparar a las empresas a las familias e instituciones

como por ejemplo abriendo una línea de financiación de noventa millónes de euros para proyectos de sostenibilidad energética un plan para instalar mil tejados solares en un año y campañas de sensibilización pero también incluyendo medidas para proteger a euskadi de los efectos cada vez más viables de la crisis climática con programas de prevención

creo que podemos decir con orgullo que es un buen acuerdo en primer lugar porque desbloquear un diálogo de sordos que en cierta manera

se demuestra que los acuerdos se alcanzan cuando hay voluntad para ello

que a las puertas de dos mil veinte tocaba explorar nuevos caminos para construir y acometer las transformaciones necesarias para que euskadi no se quede paralizado ante los retos que tenemos por delante

ante esto yo tengo que agradecer la actitud del consejero azpiazu y por

las prioridades y objetivos del elkarrekin podemos en este proceso así como entender el valor añadido

nos traían frescura e innovación para acometer las cuestiones más importantes que tenemos en la agenda política

pero no por ello dejan de ser imprescindibles y aunque muchos han despreciado este tipo de medidas creo que son una buena muestra de que este acuerdo

en ciertas cuestiones y sin duda este acuerdo también sirve para generar confianza en la sociedad confianza en que hay fuerzas políticas capaces de entenderse

y hacer que el país avance a pesar de las diferencias políticas ideológicas huyendo del y tú más y de la crítica destructiva

este acuerdo demuestra que tenemos la capacidad y la voluntad de lograr que se hagan cosas de conseguir que algo ocurra más allá del escrito hace tiempo en un guion que necesita urgentemente ser actualizado creo que ayuda a tener claro que elkarrekin podemos se preocupa por los problemas diarios de la gente y que ha venido a dar soluciones y que está a que la política vasca evolucione y avance en definitiva en política las ideas se miden por su capacidad de llevarlas a cabo y desde elkarrekin podemos siempre hemos tenido esto claro por eso hemos decidido hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para mejorar

que hace unos meses podían parecer impensables y esa es la principal tarea que tenemos los partidos progresistas ir dibujando cada día el país que queremos

estos presupuestos no son los que hubiera elaborado elkarrekin podemos en caso de gobernar pero este es un acuerdo necesario

y es tarea del gobierno pero también de todas las fuerzas progresistas contribuir a ampliar esos modelos

del país que queremos llegar a ser para eso nos trajo a la gente aquí para mejorar sus problemas ahora

al acuerdo de gobernabilidad para culminar

e incluso el propio gobierno lo han dejado claro estas últimas semanas estos presupuestos tienen como fin último dar cumplimiento de gobernabilidad a su acuerdo de legislatura así vienen a dar la razón a euskal herria bildu estos presupuestos siguen la misma senda de siempre

como era de esperar sinceramente señor martínez era de esperar en el último año de legislatura tienen las mismas bases y las mismas líneas de actuación y en definitiva

los últimos años sin nuevas improntas y sin nuevos pasos en ninguna nueva dirección hau da aurrekontu hauen errealitatea

el lema de los presupuestos más sociales un lema por cierto construido sobre una lectura bastante el libérrima de los mismos no es consuelo

en situación de exclusión social en bizkaia gipuzkoa y araba

lo son de larga duración y qué decir de las personas desempleadas de más de cuarenta y cinco años que recibieron a través de la famosa reforma

por mucho truco de magia que hagan con los números la realidad es que podemos

y ha optado por blanquear los recortes por dar continuidad a las políticas impulsadas por el gobierno de patxi lópez aquel famoso pacto

aquel pacto que sirvió para implementar políticas neoliberales como el famoso recorte

no se han movido se han movido a un espacio de confort donde las clases necesitadas realmente lo pasan muy mal ustedes están donde dijeron que jamás iban a estar con este acuerdo ustedes todos los firmantes del acuerdo

estrangulan las opciones de salir de la pobreza de cientos de vascos y vascas mientras que con la otra mano dejan abierta la puerta para que escapen los rentistas

de retornar parcialmente al país lo que sacan de él cada día por mor

a esto también le dan carta blanca los nuevos compañeros de podemos la brecha social se va ampliando las desigualdades sociales son cada vez más patentes

crecen pero ustedes siguen con recetas viejas este gobierno y sus vamos aliados cumplen el expediente en materia de política social

seguir saliendo bien en la foto pero esta foto cada día está más desenfocada porque este país pierde enteros en la lucha contra la exclusión social

mientras otros territorios avanzan con nuevas políticas

viven de las rentas y esta estrategia no les va a durar eternamente ustedes siguen utilizando y hoy mismo a la mañana lo he escuchado como logro presupuestario el peso de las partidas de carácter social algo que y textualmente es resultado del modelo de distribución competencial interinstitucional

es resultado del modelo de distribución competencial por lo tanto no es consecuencia de una elección política no es consecuencia de una voluntad política

las tendencias del momento pero en vez de escuchar a la gente a la calle para responder con políticas audaces optan ustedes por quedarse en la imagen y eso es lo que han vuelto a hacer ante la imposibilidad de usar el lema de mayores presupuestos de la historia han optado ustedes por la lucha contra el cambio climático y la perspectiva de género como imagen de marca

en realidad de marca vacía de ausencia de color total y al menos tan vacía de contenidos como está este presupuesto aurten

después de negarlo en comisión la consejera tapia que está aquí presente

por una euskadi sostenible los cien millónes y medio del tav

ni siquiera son inversión directa del gobierno vasco cuentan también unas obras de urbanización por más de cinco millónes de euros una estabilización de una ladera en erandio

por más de tres millónes de euros o un plan de renove de automóviles

ustedes han pintado de verde como acciones de política contra el cambio climático muchas partidas que son continuidad del modelo que ha fracasado en la última cumbre climática de madrid han envuelto en un manto de novedad partidas que ya se venían que ya venían existiendo y en cambio han optado por no cumplir el mandato de este parlamento el mandato de la ley de sostenibilidad energética de constituir este año una herramienta financiera

con una cantidad mínima perdón en el dos mil veinte de cien millónes de euros para facilitar las inversiones de las administraciones locales este gobierno

voluntariamente y a su vez tratan de vender como un logro el acuerdo presupuestario con podemos que hace que esa dotación de cien millónes se nos vaya hasta el dos mil veintisiete es decir posponen ustedes voluntariamente una inversión en un cambio real a cambio de un maquillaje sin fronteras de gobiernos muy aficionados a los fuegos de artificio genero ikuspegiaren inguruan jaurlaritzak saldutako produktua ere aztertzekoa da

indartu egin da baina hori da diskurtsoa besterik ez porque lo que han hecho con los pequeños cambios que han introducido en los presupuestos

de gobierno con podemos no es más que cimentar

más allá de ampliar la dotación de partidas ya existentes y por lo tanto de planes ya existentes por cierto algunos de ellos con años de ineficacia contrastada

más allá de darle la baza perfecta al gobierno para incumplir leyes de introducir pequeñas partidas para planes campañas y estudios varios sin definición y cómo no

o ejecutadas por el propio gobierno vasco como la creación de un índice de referencia de precios de alquiler cuya contratación ya está adjudicada a la upv desde el pasado mes de noviembre su acuerdo presupuestario ha sido un trabajo de encaje de bolillos para vestir un acuerdo labrado mucho antes de que los números del presupuesto estuvieran

edukitzea hori pnvko ordezkari batek zuen zuzenketen harira no tengo mucho más que decir la verdad este es el panorama presupuestario que se nos presenta un panorama que el consejero aspiazu que nos ha dejado define como realista ah barkatu

señor azpiazu define como realista responsable y ajustado al marco competencial

pareciera que este es el único ya que todo lo que sale del marco que ustedes hacen que ustedes definen y que ustedes trazan como irrealizable y fuera del marco competencial una manera

y de jugar al fuera de juego ante los que defendemos que queremos ser dueños del balón miren

aunque tampoco tiene la competencia para fijar el salario mínimo recientemente ha anunciado su propuesta de salario mínimo

que aplicará en los salarios de los propios trabajadores de la generalitat en los contratos públicos y ofreciéndolo como índice a los agentes sociales para que lo utilicen en la negociación

que no tengamos las competencias no quiere decir que la generalitat se tenga que quedar con los brazos cruzados pues pueden ustedes actuar en clave de país

o pueden seguir como siempre refugiándose en las limitaciones impuestas y lamentarse una vez más de que esto no da para hacer más

todas y cada una de nuestras propuestas tienen cabida en el marco competencial tienen cabida en el marco económico presupuestario porque son propuestas realistas

y mesuradas propuestas para defender un marco propio de país un país en movimiento un país en continua transformación

zero koma zazpi helburu izanik pero hoy ustedes aprobarán un presupuesto con unos nuevos compañeros de viaje y la verdad es que quieren hacer creer a la sociedad vasca que con estos nuevos compañeros de viaje estos presupuestos dan un primer paso

la verdad que no sé si es hacia el cielo o hacia otro lugar pero la dirección no ha variado y la postura de este gobierno tampoco un gobierno que anuncia esta semana el advenimiento de una nueva era de estabilización

y económicas la verdad es que la querencia de este gobierno por el marketing presupuestario no tiene límites y han aprovechado hasta la efervescencia festiva navideña para colar su mundo de luz y color

en el teleberri de turno todo muy propio la verdad y este gobierno sigue cómodo sigue cómodo en el valle el consejero ya sabe de lo que le estoy hablando siguen en el valle deambulando

lo que necesita es subir la montaña porque desde el valle uno nunca ve lo que hay al otro lado y a pesar de todo esto

seguimos aquí eh bildu sigue aquí con la mano tendida y con la esperanza de que abordemos

a los que nos enfrentamos la crisis de modelo energético que sustenta un país injusto el modelo de empleo que precariza y evita por extensión

no muy lejano y por último y no menos importante un modelo territorial agotado que ya solo es defendido por un rey moderado en palabras de sus nuevos compañeros de viaje miembros del gobierno

que se resiste a salir del cuadro seguimos a la espera de que abandonen la foto para trabajar con discreción por algunos acuerdos importantes para este país por nuestra parte trataremos de seguir acordando para transformar y no

permanecer en el mismo sitio de siempre los presupuestos pueden ser también una herramienta emancipadora

una ley defensiva ante injerencias o ante imposiciones externas en su mano está transitar esta senda y no profundizar en un marco agotado

ya que el fondo en el fondo como todos sabemos sigue siendo

esta intervención ya que estamos en veintisiete diciembre con dos felicitaciones en primer lugar

al consejero azpiazu en octubre nos trajeron un proyecto de presupuestos y hoy van a aprobar un proyecto de presupuestos que en el noventa y nueve coma veinticinco por ciento es exactamente

podemos ha dado su aval al noventa y nueve coma veinticinco por ciento del presupuesto que acordaron pnv y partido socialista esa y no otra es la realidad de este presupuesto y en segundo lugar desde el absoluto respeto

la coherencia y la lealtad a los principios
siempre merece ser felicitada eskerrik asko pinedo andrea

la ley de presupuestos que vamos a aprobar hoy va a ser el marco financiero y de estabilidad que va a posibilitar la creación de once mil quinientos puestos de trabajo el año que viene el marco que va a rebajar

en las inmediaciones del nueve por ciento el marco donde se va a reducir la deuda por debajo del doce por ciento el marco donde se va a mantener y se va a garantizar

y de calidad destinándose a ello más de la mitad del presupuesto y en este ámbito tenemos dos retos principales la primera mantener sostener ese ochenta y seis por ciento

ciento cuarenta y uno millónes de euros más y en educación mantener los índices record de bajo abandono escolar potenciando y mejorando aún más la excelencia para mejorar en las capas altas de ella verdad estos presupuestos serán por tanto el marco que sostendrá la apuesta del gobierno por un estado de bienestar robusto en el ámbito de la protección social tenemos seguimos teniendo un ochenta y cinco por ciento de los vascos que viven bien

sigue siendo que tenemos un quince por ciento en riesgo de exclusión social somos y seguimos estando mejor que el estado y mejor que la media europea

la robotización las grandes oleadas de inmigración que son positivas para el bienestar

hay que seguirlas de cerca porque pueden tener un efecto centrifugador

que les pueda a las cuales les pueda costar adaptarse

exigen los nuevos tiempos estos presupuestos en definitiva van a ser los presupuestos de la estabilidad económica y política de la creación de empleo y de la solidaridad entre los vascos para quienes no sean alcanzados por esta creación de dieciséis mil quinientos empleos este año y de

veintidós millónes de planes para los planes locales de empleo o diez millónes para potenciar el empleo en comarcas desfavorecidas además de todo un sistema económico que se potencia

para que la economía de euskadi sea en su conjunto pujante y ofrezca oportunidades para que siga sirviendo ese ascensor social históricamente o al menos en los últimos cuarenta años hemos disfrutado en euskadi entrando ahora en las enmiendas de voy a empezar por el partido popular

anotar literalmente alguna de las frases queremos una el gobierno quiere una ciudadanía domesticada este es un gobierno de funcionarios y para funcionarios hay mucho gasto corriente en fin se habla

y la realidad dicta todo lo contrario en este par de semanas que hemos tenido desde la última vez

hemos podido recopilar he podido recopilar unas cuantas informaciones la primera es que euskadi es una de las comunidades con ratio con un contenido ratio de funcionario por habitante y para eso

personal al servicio de las administraciones públicas lo hace en conjunción con el banco de españa y aquí se indica

funcionarios públicos en el estado dos millónes y medio vamos a redondearlo

es decir haciendo una sencilla regla de tres sale que tenemos el cuatro coma cuarenta y cinco por ciento de los funcionarios del total del estado para una población de acerca de aproximadamente cinco coma cinco y una economía del seis coma cuatro es cierto es cierto que hay que habrá que incluir factores correctivos

en todo el estado habrá que corregir el dato pero desde luego no indica que estemos ante un estado mastodóntico

la clase funcionarial de este país la segunda es que la mitad del presupuesto del señor erkoreka más de la mitad prácticamente cincuenta millónes se destinan a la digitalización de la administración muy a pesar suyo porque en sus enmiendas les quieren quitar el software informático o parte del software informático por un valor de más de tres millónes de euros este gobierno trabaja en la digitalización que es el futuro de la administración la tasa impositiva en euskadi está por debajo de la unión europea esto es cierto podíamos discutirlo también podemos hablar de que el mayor diferencial está en los impuestos indirectos y en el iva

tenemos también una tasa impositiva contenida la suficiente para mantener el estado de bienestar del que gozamos actualmente y finalmente el cuarto dato este es un presupuesto que invierte más de mil millónes de euros en inversión y lo cierto es que invertiría

con la ley de estabilidad presupuestaria aprobada en el dos mil doce si uno quiere actualizar los sueldos públicos uno tiene que elegir o destinamos ese aumento

paga de los funcionarios públicos o a la inversión por suerte en estos últimos dos años años en los cuales hemos tenido unos datos de recaudación

esquivar un poco esa ley de estabilidad invirtiendo haciendo inversiones importantes en forma de inversiones sostenibles

el último informe trimestral de la economía vasca nos muestra una economía que sigue creciendo al dos coma uno por ciento frente al uno coma tres por ciento de la zona euro con una tasa que sigue bajando lo he dicho antes bajaremos al nueve coma tres el año que viene

y con una industria que sigue creciendo al cero coma siete por ciento es cierto que hay sectores como servicios que crecen aún más pero oiga

esta costumbre de estar siempre a lomos del caballo del apocalipsis porque lo cierto es que a corto plazo en doce meses de plazo siempre tenemos que tener previsiones

concienzudamente desde la ciencia económica que es una ciencia muy compleja

previendo crisis continuamente yo lo desterraría un poquitín porque no importa lo cara que sea la corbata del economista que lo diga nadie puede predecir lo que va a ocurrir dentro de dos tres cuatro años hay que

hemos pasado por una economía que ha galopado en el dieciocho y el diecinueve

a raíz de la recuperación económica son dos años también en la que ha habido una cierta recuperación del poder adquisitivo algo que se venía requiriendo también por parte del gobierno

un presupuesto ajustado una tasa impositiva ajustada también y una inversión

entre las enmiendas que han reservado yo ya les eché en cara aquí el lunes pasado que no muestran ese supuesto modelo de sociedad alternativo por cierto por comparar los datos de los estados unidos por ejemplo en el ratio de personal funcionario y habitante no dista tanto

para comparar porque ustedes bueno hacen un discurso en el cual

la administración y utilizan ese eufemismo de gasto corriente pero es que el gasto corriente es básicamente sueldos de funcionarios y mantenimiento de edificios públicos cosa que en fin díganos de dónde se puede recortar no nos lo dice nunca por tanto rebaje un poco la esta solicitud porque ya sé

no me las van a contestar en el caso de la renta de garantía de ingresos bueno y de sus

en fin la tasa de fraude y esto nos tenemos que basar siempre en los datos que dan

en los perceptores de la rgi es menor al uno por ciento

la obligación de no hacer discursos demagógicos y de bueno atenernos a la realidad y la realidad es que

los perceptores de la renta de garantía no defraudan más que los que todos los ciudadanos cuando cambiamos las ventanas o cuando llevamos el coche al taller

no es mayor por tanto la estigmatización caer en ese precipicio de estigmatización es muy peligroso este gobierno y nuestro grupo seguirá haciendo todo lo contrario

en cuanto a las enmiendas que ha dejado vivas euskal herria bildu bueno ha dicho usted que los compañeros de viaje son malos no mire hace

y nos afeaba al pnv que nuestros compañeros de viaje que en aquel momento en la aprobación de los presupuestos eran el partido popular y el partido socialista

incumplen la ley de dependencia que sostienen el estado fallido que es españa por cierto un estado que a lo mejor ustedes ahora apuntalan

en esa nueva faceta facilitadora que están mostrando y con esas sonrisas

en las moquetas del congreso pero yo este año

nos echan en cara que ahora pactamos con el tercer partido de ámbito estatal que es elkarrekin podemos y yo vamos a ver en este parlamento de cinco partidos resto al parlamento

estatal el partido popular estatal y elkarrekin podemos estatal con quién se pacta con quién queda elkarrekin podemos digo

es que han estado cuarenta años ausentes berriz

inondik inora para aprobar estos presupuestos nos han pedido tres grandes cosas que son

le su compañero casanova que no lo habían aplicado en navarra cuando aprobaron

y que no está en manos del gobierno les traje tres artículos el lunes pasado

de llamamientos del gobierno a que sea actualizaran

en euskadi pero es cierto que en el dieciocho y en el diecinueve han subido por encima del ipc

ese horizonte último de recuperar los sueldos que había antes del dos mil doce pues bueno ya se está dando después nos solicitan también

las tres principales cosas que nos piden no son competencia ni de esta cámara ni de este gobierno

facilitadora en madrid lo cierto es que tienen que dejar esa actitud de adolescente insolente que mira

lo que tienen que hacer ahora que tienen cinco representantes en madrid que pisan la moqueta después de algunos años fuera y que tienen esa actitud facilitadora que se evidencia lo vuelvo a decir en sus sonrisas y en su buena disposición

investidura del partido socialista y el partido popular es presentar

conseguir cosas para el país y en segundo término presentar una hoja de servicios a este país una hoja de servicios cuál es la que tiene que presentar en los últimos

ambos planos han conseguido un calendario de traspaso de transferencias pendientes

con el ipc especialmente y por encima del ipc para las viudas

el gobierno ha conseguido una renovación del cupo un acuerdo para la estabilización financiera

he apuntado en su intervención unas cuantas cosas por ejemplo se creaba empleo de mejor calidad del que se crea ahora

que definen el empleo son mejores que ahora el único discutible

discutible puede ser la tasa de indefinidos pero todo el resto la tasa de empleo se va a acercar al nueve coma tres el año que viene

esperemos continúe también en el veinte y la evolución de los contratos indefinidos marcó el año pasado un récord

un récord por tanto hombre yo creo que no depende tanto de quién es el socio del gobierno el socio presupuestario del gobierno sino también de las políticas que se llevan a cabo

dice usted que esto se podría fraccionar el pago en varios años

la contabilización se hace en un mismo en un solo presupuesto lo cual le hace un roto a cualquier presupuesto y desde el punto de vista más filosófico lo cierto es que hemos acordado con elkarrekin podemos que se lleve a la negociación colectiva y que se lleve a futuro porque

que sufrió la sociedad vasca no hizo distinciones no hizo distinciones y por tanto hay aún quedan algunos puntos por ejemplo

donde aún se puede recuperar eso hay que llevarlo a la negociación colectiva y hay que mirar a futuro porque con carácter retroactivo si empezamos a tapar lo que en aquel momento se perdió pues prácticamente no había presupuesto durante cinco años para ello no en ayuda a las familias ya le dijimos

hace la semana pasada el lunes de la semana pasada que prácticamente se ha duplicado desde el dos mil doce yo les traje los datos este año son aproximadamente ochenta millónes de euros

dos mil doce y en el tema de las haurreskolak que es un tema transversal también importante

se aumentan las ayudas en los presupuestos del dos mil veinte con ese objetivo

el abaratar el servicio en el canon del agua no sé si

de este debate presupuestario también tuvimos este debate el viernes pasado lo cierto es que es un tema debatido y rebatido lo cierto es que no se suben los impuestos lo que se hace es

lo que va a ocurrir es que se va a pagar porque actualmente la ley no se cumple y una de las tres patas que es el uso doméstico de las captaciones de agua de ríos y manantiales no se está cumpliendo pero bueno esto ya lo debatimos largo y tendido

y en el caso de los trienios yo ha tergiversado un poco lo que se hace en realidad

alto cargo del gobierno la propuesta es que se les pague a altos cargos del gobierno que son funcionarios de carrera

normalmente normalmente la retribución no es el principal atractivo

se meta a alto cargo no es el principal atractivo por tanto hagamos un discurso responsable y no saquemos esto para afearle

de debate presupuestario al nuevo socio a dificultarle al nuevo socio el apoyo a los presupuestos el día de hoy es un día importante ya digo

unos presupuestos buenos para euskadi que van a sostener la pujanza económica del dos mil veinte la estabilidad económica la creación de empleo lo vamos a hacer con un nuevo socio que se aviene a pactos

de trascendencia y bueno más allá

lo que vamos a demostrar hoy es que la política en euskadi es diferente y que somos capaces de llegar a acuerdos entre
trasversales entre diferentes eskerrik asko eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señora castelo sigue usted con el mantra del duelo

en estos año y medio cutre que llevamos de este gobierno la única ley medianamente importante

que es la ley de cooperativas digo por comentar esto de que nos negamos a hablar y a pactar y esto del arte de

cuando dos quieren dialogar cuando alguno se niega porque ya tiene un pacto hecho con otros para qué hablar con otros ni de impuestos ni de nada que es lo que ha pasado aquí

el señor martínez nos decía hoy no se entiende que estemos aquí sin ver lo que pasa fuera pues claro lo que ha pasado fuera hace ya seis meses

porque aquí están los cuatro grupos que son socios del señor sánchez son todos socios allí

en lo importante en lo que de verdad cuenta los cuatro grupos que hay aquí son socios

pero en navarra qué si están apoyando al mismo gobierno anda que no psoe pnv y podemos lo mismo

no nosotros sí tenemos una enmienda señor arruabarrena nosotros sí tenemos una enmienda

gratis no que cueste menos que sea gratis cosa a la que ustedes se oponen hombre yo señor arruabarrena yo por no

la importancia del país vasco y su economía en españa en los últimos años y cómo va así en población

esta es la realidad cuando el pnv

éramos los primeros ya no somos los primeros señor lehendakari lo siento mucho hombre es evidente que no solo ha participado usted venimos ya de cuarenta largos años verdad y vamos así pero claro

el cuadro macroeconómico oiga este gobierno fíjese usted ha tenido exceso de ingresos

lo que ha dado lugar a un superávit de más de dos mil millónes de euros que se dice pronto

de euros sabe usted dónde ha ido el dinero a consolidar el gasto corriente y sabe para qué sirve para eso que se llama clientelismo

pero a los que no son sus clientes muy mal que por cierto la mayoría no son sus clientes me dice vamos a potenciar con estos presupuestos la educación

a ver somos la comunidad autónoma que más gastamos en educación y de las que peores resultados tiene en educación

por su ausencia sí nuestras enmiendas han sido rechazadas me habla de gratuita y universal

por qué hay que pagar porque en el acuerdo que ustedes tienen reconocen que es un derecho de los padres a elegir la educación de los hijos

y por qué el cincuenta por ciento de los alumnos cuestan un tercio del presupuesto y el otro cincuenta por ciento que es la pública dos tercios del presupuesto

usted cree que es justo no sé le pregunto

y en este presupuesto esa diferencia se incrementa

se incrementa y también evidentemente los sueldos de los profesores y profesoras de la concertada pero ese es el modelo social que ustedes están eligiendo y que han cambiado

oiga mire yo le voy a dar otro dato por qué no me cuenta usted cuántos personajes tenemos contratados en las empresas

semipúblicas participadas fundaciones organismos entes y demás súmemelos y eso sin contar a los de las diputaciones y ayuntamiento súmemelos a ver cuántos salen

si la mitad del presupuesto es para subcontratar fuera lo que teóricamente por cierto a dedo también es clientelismo

de cosas que teóricamente tendrían que hacer los funcionarios entra dentro del porcentaje de funcionarios o no entra dentro del porcentaje de funcionarios de qué me está hablando oiga yo no he dicho en ningún momento que estamos en crisis económica pero como vamos a estar no estamos creciendo como estábamos creciendo

eh en una crisis económica no se baten los récords de recaudación de impuestos bajan en una crisis económica bajan y me habla de la rgi la tasa de fraude oiga es fraude cobrar la rgi y trabajar en

porque es lo que fomenta este modelo si se lo he dicho antes

tu sueldo en doscientos o trescientos euros trabajando el mes o no trabajando este es el modelo oiga ustedes y nosotros

sacamos el índice de la rgi de la referencia al salario mínimo por qué era un modelo qué han hecho ustedes ahora

si esto es lo que están haciendo ustedes con este presupuesto que es un cambio de modelo si no lo quiere ver no lo vea los demás lo vemos perfectamente

en los contratos indefinidos oiga vamos a ver es que el contrato de calidad tiene dos patas una a es indefinido y b el sueldo

no se lo voy a discutir más me dice adostuz

por cierto tanto que se habla aquí de discriminación verdad y de las enmiendas moradas verdes azules y amarillas

no dicen que han movido doscientos millónes de euros este año en el presupuesto y al señor azpiazu no se le ha descuadrado ningún cuadro macro pues esto era menos

esto es menos cincuenta millónes menos el total y la proposición de ley que está en trámite

no sé cuál es su sí sé cuál es su problema sí se cuál es su problema que evidentemente no quieren revertir esos recortes sociales que se hicieron

en la toma del río del pantano de lo que usted quiera cómo va a pagar más el que más consume

que era la función de un impuesto ecologista ahora es

porque ustedes dicen que va a subir coño subir de uno a siete o de dos a siete es más del cien por ciento y más del doscientos por ciento hasta donde yo sé hombre y lo de los trienios a ver yo no sé si usted se ha hecho un lío o no se ha hecho un lío

también cobran trienios esta no es una medida para los funcionarios

para que los no funcionarios puedan cobrar también trienios en el gobierno si usted fuera funcionario y estuviera aquí en el parlamento vasco cobraría su suelo

porque en este país los funcionarios es una gente que sí tiene derechos

y eso es lo que los señores de elkarrekin podemos están aprobando por cierto señor martínez no me ha contestado qué se siente

y al más corrupto de aquí aquí en cualquier caso como se me acaba el tiempo

y que el año dos mil veinte por lo menos nos deje como estamos eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

la verdad es que claro

de las intervenciones tanto del partido popular como la de eh bildu

o cuál es su contenido porque claro de treinta minutos que ha utilizado la señora pinedo para explicar la posición del partido de su partido ha dedicado veintisiete minutos exactamente veintisiete minutos a criticar la actitud de elkarrekin podemos bueno de una parte de elkarrekin podemos que yo creo que ha tenido un poco de retranca esa parte final yo no estaría tampoco muy contento con que me agradecieran desde una tribuna verdad una posición

día a día y ha dedicado tres minutos tres minutos para el cambio de modelo la alternativa que supone

una alternativa que se les debió de olvidar en el año dos mil diecinueve cuando arremangándose la patita se pusieron ustedes a negociar con el gobierno vasco los presupuestos porque de todo eso que me ha contado aquí

creo que han sido siete puntos salario mínimo de mil doscientos euros en todas las contrataciones públicas un plan de choque para jóvenes un plan de choque para larga duración un plan de choque para emprendimiento les encantan los choques

cuidadoras un complemento de pensiones una renta de emancipación universal para los jóvenes un cero coma siete de cooperación al desarrollo es que todo esto todo eh todo se les olvidó el año pasado cuando entraban a negociar de temas verdes

se centraron en dos cosas un porcentaje de subida de la rgi un porcentaje de subida de la rgi porque el smi ni apareció

este año y propuestas concretas en programas de empleo y punto y punto con el principio de realidad de intentar arremangarse para decir que quiere ustedes ser cómo ha dicho eh bildu sigue aquí me venía la canción

porque otra cosa a mí no creo que ustedes den el paso llevan décadas ahí décadas ahí y nunca mano tendida pues la tendrán tendida lo que no sé también si es para saber si llueve o hace sol pero desde luego

para eso que tanto les preocupa de las necesidades de los retos del futuro de las incertidumbres para eso nada ahí en el confort de sus asientos

de la cadena ya saben estatal somos un partido estatal así creo que nos acaban de definir hoy pues allí estaba el oso pardo hibernando y a ustedes eso le canta yo del ñu del serengueti

lo llegué a entender por tanto a mí me hace mucha gracia porque dicen ustedes yo quiero ser el dueño del balón

los ciudadanos y resulta que no se los entregan los ciudadanos no les entregan a ustedes el balón para hacer todo eso que a ustedes parece que se les pone en la cabeza lógicamente cuando están en la oposición que cuando están en el gobierno pregúnteselo cuando estuvieron en gipuzkoa pregúnteselo cuando estuvieron en navarra

el balón cambia de color cambia el espacio de juego y a partir de ahí ni el smi este vasco

para nada los mil doscientos mínimos de contratación alguna otra cuestión verdad tenemos como aplicar los convenios

center o contratar empresas que estaban en valencia para atender servicios de

con eh bildu que la verdad no sé si merece mucho más la pena porque claro como no se han molestado ni en comisión ni aquí en defender sus propuestas algo que por cierto también ha pasado con el grupo popular el grupo popular en la comisión en todas sus enmiendas en las seiscientos y pico enmiendas usó una táctica

damos por defendidas nuestras enmiendas damos por defendidas nuestras enmiendas y aquí usted ha salido y no ha defendido sus enmiendas

no era una cosa que afectaba por ahí en un ayuntamiento se condenaba por financiación ilegal a un partido político que en aquel momento estaba en el gobierno
a un presidente del gobierno que se le isiltasuna

ruiz de arbulo isiltasuna señora presidenta yo sin ningún problema es lo que tiene
ese duelo es lo que tiene no querer reconocer y es lo que tiene querer maquillar verdad

lo que hay porque ustedes hacen biribilketas me dicen hemos aprobado una la de cooperativas si no

de toda la insistencia que tuvo con el sector y de introducir las enmiendas y de estar en una negociación como digo yo sincera

otras nueve o diez en las que estamos pues bueno tonteando día sí día también en las ponencias sin argumento ninguno no nos señale usted para allí le señalo para allí si yo tengo algunos compañeros suyos con los que estoy en ponencia entreteniéndome desde hace aproximadamente dos años sin avanzar mucho en los argumentos porque no los tienen simplemente es una cuestión de no porque no y no es que es no y en esas estamos y llegamos aquí y décimos pues cuestiones que son totalmente pues incoherentes

unos meses estábamos en una situación terrible dramática claro tenemos más recaudación en irpf un impuesto

desde aquel pacto con ustedes con ustedes por cierto en el que estábamos los dos de forma personal

sea lo que sea en el dos mil veinte datos del diecinueve análisis y el mismo procedimiento que se utilizó en el anterior y claro resulta que la recaudación por el irpf

porque hay más personas pagando impuestos y hay mejores salarios

no es otro el misterio de la recaudación y eso qué significa pues que hay más empleo y de mejor calidad ese es el argumento que usted no es capaz

la renta de garantía de ingresos es un sistema de protección social para cuando tienes dificultades para cuando tienes problemas es un sistema de protección que lo que hace es que las desigualdades esas que a ustedes no le importan porque quieren que los ciudadanos sean libres con lo que tengan y elijan con lo que puedan

de vivir en la indigencia de tener cubiertas sus necesidades básicas y usted sabe como yo sé que desde que se inició la legislatura hasta ahora hay menos perceptores de la rgi por tanto es mentira el argumento que dan de que la gente se quiere cronificar ahí

a complementos de pensiones de pensionistas que tienen una pensión baja que es complementada con la renta de garantía de ingresos y que la parte activa entra y sale del sistema

por tanto la criminalización que ustedes pretenden hacer de la renta de garantía de ingresos es totalmente demagógica y la verdad es que creo que flaco favor nos hace con los nuevos protagonistas del ámbito político esos a los que ustedes

en algunos sillones de algunas instituciones yo en cualquier caso no comparto su modelo no comparto bajar impuestos y he recogido frases que ha dicho

no comparto que no haya un salario mínimo interprofesional creo que los trabajadores tienen derecho a tener un mínimo

que realizan no comparto que tenga que haber menos prestaciones no comparto que tenga que haber menos gasto público no comparto que no tenga que haber servicios para todos no comparto que elija solamente el que pueda quiero que puedan elegir todos libremente sin tener en cuenta cuál es su situación económica

critico tanto el fraude fiscal de empresas de autónomos o de particulares como el fraude que se pueda realizar en las ayudas tanto de emergencia social como de renta de garantías o de cualquier otras ayudas que pueda otorgar una administración pública porque el sistema está para quien lo necesita no para que se aproveche

al fraude fiscal le dan menor importancia y de vez en cuando en esa economía sumergida que tanto le preocupa y en ese fraude fiscal que tanto le interesa

y eso es lo que por ejemplo gente que no tiene más que setecientos euros que a usted le parecerá estupendo una cantidad divina

en otras instituciones y en otros ámbitos no les llegaba con el sueldo de parlamentario no les llegaba con el sueldo del cargo en el que estaban ocupando y recibían sobresueldos

por tanto no tienen ustedes ningún derecho ni ninguna moralidad para poder ni ninguna ética para poder venir y criticar aquí que setecientos euros

para trabajar y vivir eskerrik asko castelo andrea elkarrekin podemos

eskerrik asko presidente andrea bueno empezando por el señor damborenea brevemente

el modelo de país que quiere pero lo que no sé si usted tiene tan claro es que lo que defiende usted y que lo que defiende su partido está muy lejos del consenso social que existe en euskadi y que esta estrategia de ir

y va a acabar dejándole en los márgenes de la política vasca el mundo ha cambiado

en los años noventa ni su discurso es creíble ni su discurso es constructivo es incendiario

y es que está además tan lleno de falsedades

continuando por la señora pinedo que no creo que sea la persona más adecuada para meterse en las cuestiones internas de nadie cosa que creo que está

por cierto su discurso ha sido una réplica del argumentario de euskal herria bildu el que ha desplegado estas semanas para criticar legítimamente desde una manera feroz e incomprensible para criticar un acuerdo

del que se bajaron en el último minuto en el último minuto o sea que tan mal no fue

que están en el acuerdo que ustedes ni siquiera pusieron encima de la mesa de la en su plataforma de negociación porque qué negociaron en políticas feministas

o qué negociaron en medidas contra el cambio climático nada

porque hay una realidad irrefutable hay una realidad irrefutable que es que gracias a elkarrekin podemos las personas perceptoras de la rgi van a cobrar cuarenta y nueve euros más en dos mil veinte cuánto habría mejorado su capacidad adquisitiva gracias a euskal herria bildu cero euros señora pinedo cero euros

de dar lecciones sobre esta cuestión de quién trabaja para mejorar la vida de los que peor lo están pasando porque cincuenta euros para una familia que no puede llegar a fin de mes es una mejora significativa suficiente obviamente no que el sistema es injusto y no sirve para salir de la pobreza y necesita reformarse obviamente estamos de acuerdo

presupuestario y mucho podríamos hablar aquí del papel que ha jugado cada uno en el otro debate

y está claro que son muchos que son variados y que llegarán a muchas personasle parece mal a usted que se abaraten las haurreskolas o que haya un fondo contra la ludopatía

muy mal supongo que no le parecerá cuando tras conocerse el acuerdo inmediatamente después

pero es que esa es la diferencia que ustedes hacen declaraciones de intenciones y nosotros medidas efectivas

porque no sé creen que es una mala noticia que hayamos hecho que el gobierno tome medidas de prevención y protección contra las violencias machistas

y que son reclamadas como el punto de partida esencial para articular políticas efectivas quizás es que euskal herria bildu no ve lo que le va a cambiar la vida a las familias que saldrán beneficiadas por los centros de salud mental para niños niñas y adolescentes

como el partido popular sinceramente en su crítica legítima y respetable insisto creo que hay muy poca política y mucha demagogia

y no creo que deban hacer lecciones sobre principios y valores los principios están para usarlos para que cobren vida

si ustedes quieren preservarlos en una urna de cristal es su decisión pero no cuestionen la voluntad de mejora

aunque sea despacio aunque sea en menor medida de lo que desearíamos pero en el actual momento político hay dos opciones quedarse dando lecciones sobre cómo deberían de ser las cosas

aunque sea de una manera menos transformadora de la que nos gustaría pero es que usted lo ha dejado muy muy claro en su intervención ha dejado muy claro cómo entiende la política

ha dicho que quieren jugar con su propio balón ese es el problema

y que si las cosas no van como a ustedes les gusta coger el balón se lo llevan lo pinchan depende del momento

y sinceramente le digo que con esa actitud esta sociedad no va a avanzar y difícilmente vamos a poder construir el país del futuro porque como he dicho antes

es de ser brújula para seguir transformando el mundo día a día y ya lasaiago

pero mire sabe qué le pasa a usted se lo he dicho en otras ocasiones usted no estuvo en la negociación presupuestaria en ninguna en ninguna y usted no escuchó las propuestas de eh bildu porque estaba esperando

lo que estos señores y señoras les digan este es su problema señora castelo que usted rubrica lo que otros deciden y entonces no lee las propuestas de eh bildu

es el suyo hace mucho tiempo se lo dije mire usted me dice que nosotros nos quedamos

que algunos estamos todo el día moviéndonos y ustedes donde están muy cómodos es debajo de esa mantita esperando

que estaba tejida de puestos muy interesantes colocados todos en el gobierno vasco esa es la mantita que ustedes utilizan y esa es la mantita que ustedes tienen miedo de perder

la autoría de este presupuesto porque ese es el problema que tiene el partido socialista nada más nada más

sobre el acuerdo presupuestario porque de todo hay que leer en esta vida más allá de literatura y sabe qué ni un rastro ni rastro del borrado de los recortes que ustedes decían que iban a quitar del partido popular pero ni uno ni uno ni uno ni uno mire

mire cuatro por ciento de incremento en la rgi me dice usted mire

cuatro por ciento en el articulado de la ley económicamente

patatero ah porque ustedes aspiran a que haya menos perceptores pero hay una cosa que se llama

y ustedes no lo han hecho señor martínez estoy en mi turno de palabra otra cosa haurreskolak me dice usted

le parece mal que abaratemos las haurreskolak no

y no tenga reflejo presupuestario sabe usted por qué no está ahí en el reflejo presupuestario la reducción del diez por ciento

porque eso es una enmienda a la totalidad porque eso es una enmienda a los ingresos y por eso ustedes no lo han hecho pero entonces dónde queda la reducción de los ingresos

porque mire el consorcio haurreskolak en los presupuestos tiene ocho millónes

un diez por ciento de eso ustedes no lo han puesto en los presupuestos no sé pero la mayoría de ese dinero se destina a pagar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de haurreskolak evidentemente tendrán otra vez que hacer ustedes encaje de bolillos porque que ustedes no sepan no hagan esto pues mire igual hasta me lo puedo creer porque se les ha podido pasar

que esto tenía que estar en los presupuestos en las enmiendas presupuestarias y el incremento de la rgi tenía que estar en las enmiendas presupuestarias y ustedes no lo han puesto porque entonces

que no parecer tan mal bajarlo porque hemos metido algunas propuestas va a apoyar podemos la reducción de las cuotas de las haurreskolak para los sueldos

lo va a apoyar elkarrekin podemos porque si usted me dice que está de acuerdo en rebajar las cuotas de haurreskolak entiendo

aplastante que usted va a apoyar la propuesta de euskal herria bildu cuando venga a debate a este parlamento estoy segura no tengo ninguna duda de que usted la va a apoyar mire hoy me hablaba de un discurso y yo ha habido un momento que no sabía si estaba escuchando al señor martínez

porque ha hecho usted el mismo discurso que el partido socialista viene haciendo en este parlamento respecto a eh bildu durante un montón de años que si no estamos que si

hori agerikoa da usted no pensaba que la interlocutora hoy iba a ser yo

las cuestiones que ha dicho pues mire igual para

sus maniobras en madrid pueden ser válidas pero en este país no mire cuando usted dice que pisamos moqueta y todas estas cosas y tal que a ustedes les queda muy bonito no porque que son hasta graciosos lo que pasa es que no tienen ni repajolera gracia en general cuando intentar hacer un chiste pero qué le vamos a hacer debe estar en el adn del partido pero mire usted

hoy es el aniversario de la muerte de un compañero mío de un compañero mío sabin intxaurraga que fue miembro del gobierno vasco sabe usted

pues que la ley de partidos de algunos de los que usted ahora mismo

aquello no pudiera ser no pudiera seguir y no se pudiera trabajar aparte de lo que su partido hizo dejando en un cajón un plan ibarretxe que evidentemente ya no era interesante para los intereses del partido nacionalista vasco mire cuánto hemos tardado en hacer nuestras enmiendas

que su gobierno en hacer los presupuestos sabe por qué porque su gobierno ha dedicado

porque la mayoría de las propuestas son las mismas y las memorias incluso algunas de ellas tienen los mismos errores que en el documento del ejercicio diecinueve incluso ortográficos y

exactamente los mismos errores ortográficos por lo tanto no me venga usted

omen da además el otro día utilizó un término bastante poco

oportuno ocurrencias o no me acuerdo cómo era mire

ese fondo fue aprobado en este parlamento por mayoría absoluta es más

eta zure partiduak ez du ezer jarri eso es una ocurrencia no es una elección política y ustedes han elegido no hacer lo que dice este parlamento ustedes han elegido no cumplir

con aquel acuerdo partido socialista partido popular de no dar cumplimiento a la ley

y la verdad mire señor martínez en ese alarde de medidas que ustedes han introducido

es la redefinición de lehen aukera también sí ayer salió ayer en el boletín oficial del país vasco salió la convocatoria del año que viene

de la contratación indefinida que ustedes dicen que van a primar ni palabra quince meses en caso de contratos indefinidos eso en mi pueblo no es contratación indefinida de los

referencial que cada uno lo puede interpretar como le venga en gana

porque esto ya sé yo de dónde viene ya se lo he escuchado previamente al gobierno cero patatero porque para los ciclos formativos de grado medio y formación profesional y etcétera el salario

pagas extra incluidas es decir de mil euros brutos al mes

y así la primera la primera cuestión que ustedes han pactado la primera cuestión que ustedes han pactado y ha tenido traslado a la actividad de este gobierno se ha quedado en agua de borrajas

largo y tendido mire el otro día

en relación a la valoración de las enmiendas que hacen los partidos del gobierno el otro día en el debate presupuestario de las enmiendas parciales

y mire la verdad es que yo tenía muy claro que su criterio de valoración de las enmiendas dependía de si el viento venía del sur o del norte

a ustedes les da exactamente igual y allí me dieron ustedes el ejemplo perfecto las enmiendas del partido popular que vienen siendo vienen mantienen la misma lógica

y la misma el mismo camino y su representante decía estas enmiendas no son enmiendas para mejorar la calidad del empleo

este es el rigor del partido nacionalista vasco porque estas enmiendas que son exactamente las mismas que las del dos mil diecisiete variaciones varias pero la dirección es la misma ustedes decían que eran fundamentales para el devenir del país

del país y que venían a responder siempre al bienestar del país ustedes con el partido popular y con el partido socialista

haciendo aprobando enmiendas que servían para el club de petanca para el coro del pueblo de turno y para hacer rotondas en los pueblos donde ellos gobernaban

eskerrik asko bueno la realidad es cada vez más compleja y si simplificamos mucho

en la que luego es imposible intervenir y hacer políticas públicas efectivas y por eso yo le he valorado tanto hemos valorado desde nuestro grupo tanto que elkarrekin podemos entre a formar parte de los grandes acuerdos de país porque entre otras cosas de la simplificación de los discursos y le avienen a la realidad del país es un paso importante señor damborenea

usted dice que hay mucho ente sub ente chiringuito en fin en sus enmiendas hablo de memoria

y creo que ninguna más le recortan una cuarta parte del presupuesto público a e i te be y más allá de eso no suprimen ningún

cada vez que trabajen las enmiendas habla de que

oiga pues si alguien nos adelanta bienvenido sea ninguna envidia

por lo pronto actualmente en prácticamente todos los indicadores solemos quedar si no el primero entre los primeros y en todo caso una reflexión

que invierte y que pasa todo por el centro del estado

con esa estructura de estado radial que apuesta solamente por el centro nosotros tenemos un gran escudo que es el concierto económico pero a todos aquellos que no la tengan

con esas apuestas y con crear caballos ganadores en el estado

es un derecho subjetivo aprobado por ley en este parlamento y el hecho de que se destine más o menos dinero cada año

no de una mayor o menor apuesta lo que se hace es modificar la cantidad por perceptor y el año que viene subirá un cuatro por ciento y sí

en el tema de los trienios lo que ustedes dicen señor damborenea lleva a error porque lo que se hace aquí

y de personal público lo que se va a hacer el año que viene es que esta discriminación se termine y por tanto es algo positivo y en el modelo educativo el modelo educativo que sostiene el gobierno es el que eligen los padres que es

a la pública pero las obligaciones de una y otra no son miméticamente iguales y por tanto es de lógica que la financiación no sea miméticamente igual

su financiación y seguiremos actualizándola en años sucesivos y le corrijo ya que me ha corregido usted en el tema del personal público

millónes de euros y se ha debido a la regularización financiera que fue algo extraordinario que se dio en el dos mil diecisiete en cuanto a eh bildu

meterme en la cama no mire no se ponga épica con recuerdos a compañeros que ya no están y demás creo que ha estado un poquitín fuera de lugar yo cuando hablo con eh bildu hablo con eh bildu y la mayor

lo tiene partidos que históricamente han estado en la política vasca además de eusko alkartasuna

con un deseo que es el que nos ha lehendakariak bidali digun